vemos que tenemos un informe científico técnico del ministerio de sanidad del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias del quince de enero donde podemos leer diferentes apreciaciones sobre la enfermedad de

podemos leer cuestiones como por ejemplo un porcentaje de personas describen síntomas prolongados y recurrentes durante semanas o meses tras el primer episodio de covid diecinueve independientemente de la gravedad de este aunque aún no se ha definido con precisión lo que entiende por covid persistente

parece claro que se trata de una entidad que afecta a un gran número

sanitario y social en la pandemia y otro ejemplo los síntomas y signos referidos por las personas que padecen covid persistente son extremadamente

al síndrome en cuanto a su diagnóstico y su requerimiento de atención sanitaria de carácter multidisciplinar los síntomas descritos más frecuentemente por aparatos

lo que se recoge en la tabla podría seguir pero

explicaciones recogidas en documentos técnicos pero lo que quería dejar claro es que la enfermedad covid persistente está reconocida constatada mientras que en nuestra comunidad se quiere tirar hacia adelante como si no existiese dejando de lado

a cientos de personas por no decir miles de personas por qué zergatik agian izango da hemen

beste batean posible izango dela bueno la realidad del covid persistente

negar que está ahí tuvimos ocasión de oír al colectivo de pacientes del covid persistente en la comisión de salud hace unos meses y la verdad pues fue muy ilustrativo en relación

aguda de la enfermedad sin duda para estas personas no solo no acaba todo cuando pasan dicha fase aguda salen

donde han pasado el periodo correspondiente de curación sino que luego persisten

compleja que afecta también a varios o múltiples órganos y es sistémica por lo tanto podemos decir claramente que la vida de estas personas que digo que los síntomas del covid no finalizan cuando termina la fase aguda

alterada su día a día no solo el de estas personas sino el de sus familiares la oms ha reconocido la gravedad de la enfermedad y recomienda

medidas específicas para atender las necesidades de estos pacientes desde el grupo que represento tenemos que decir que transcurrido un año

de la pandemia y estando todavía inmersos de lleno en ella actualmente

igual no tanto en cuanto a la mortalidad de ciertos colectivos como las personas mayores hoy hablábamos de novecientos cuarenta casos ayer de

casos también nos ha llevado después de este año como decía a ver la necesidad de los enfermos que

al covid yo creo que es importante y creemos desde este grupo y así hemos presentado la enmienda correspondiente incidir sin ninguna duda en investigar las causas de la persistencia de estos síntomas el hacer un diagnóstico correcto que permita identificar síntomas persisten y sobre todo proporcionar desde los sistemas públicos de salud en este caso

el tratamiento y el seguimiento adecuado de estos pacientes y sobre todo con el objeto de mejorar

incidencia posible como decía en el día a día de estas personas de estos enfermos algunos de los cuales nos acompañáis

sí que coincidimos con algunos planteamientos que nos hacía eh bildu en su propuesta inicial pero sí que entendíamos que había que incidir en algunos de forma más exhaustiva y que otros también corresponden más bien a otros ámbitos competenciales

en garantizar un diagnóstico precoz una asistencia adecuada

pacientes de los pacientes con patología covid por otra parte sí vemos necesario y en este punto sí coincidimos con la proponente en incorporar en los diferentes programas y planes formativos todas las actualizaciones e información sobre esta enfermedad

investigación y en las causas de la enfermedad covid persistente en relación a la enmienda de los grupos que apoyan al gobierno tengo que decir que también tenemos puntos de coincidencia pero no ha habido posibilidad de aproximación en esta dinámica que estamos que parece ser que los asuntos que tienen que ver con la salud que atañen a los vascos no podemos acordar

coincidentes y yo nuevamente pues lo lamento nosotros obviamente no vamos a votar en contra ni de la iniciativa

gracias señora presidenta bueno en primer lugar aprovecho también para

en el parlamento un año después más de un año después de que se diagnosticara el primer caso de covid todavía

incógnitas en torno a esta enfermedad y una de ellas también es la referida al denominado

y que todavía tenemos que saber bastante más de ello y como siempre esto supone un gran problema

cuestiones en un espacio político como es el parlamento vasco porque son cuestiones que aún causan muchas dudas también en los especialistas y por tanto sobre las que no tenemos ni podemos aportar desde el ámbito de la política certezas por tanto nosotros desde el grupo

no vamos a ser categóricos en este debate y vamos a huir además de cualquier tipo de postura maximalista fundamentalmente porque en este ámbito aún se tienen muchas dudas en el ámbito científico que es el que debe primar en torno a este tipo de cuestiones

covid por resolver no está reñido con tratar de ofrecer a aquellas personas que a día de hoy están sufriendo alguno de los múltiples síntomas asociados a la covid persistente y eso es lo que tratamos de hacer en la enmienda que hemos

el soporte de seguimiento de los pacientes que presentan secuelas y persistencia de síntomas de covid diecinueve impulsar para estos pacientes un seguimiento en consultas de las diferentes especialidades relacionadas la realización de pruebas complementarias necesarias para el correcto diagnóstico el seguimiento y soporte

proyectos de investigación sobre la persistencia desde la atención primaria

que sí podemos abordar en el ámbito de nuestras competencias y que pretenden aportar soluciones concretas a quienes sufren las secuelas de los síntomas del covid hemeretzi les decía que no íbamos a ser maximalistas porque

sabemos que hay personas que sufren la prolongación de síntomas en el tiempo tras superar aparentemente la infección

sabemos que esto puede afectar a personas de cualquier edad aunque bastantes estudios apuntan que el resultado de la afección es mayor en mujeres de edad media sabemos que se han descrito un gran número

generales respiratorios digestivos neurológicos cardiovasculares también sabemos que pueden fluctuar o persistir en el tiempo empeorar con el esfuerzo físico y con el esfuerzo mental

limitación de la capacidad funcional y sabemos que todo esto produce un impacto elevado en la calidad de vida ámbito laboral y social de las personas

todas estas cuestiones han sido ya recogidas como se ha comentado en el documento oficial de información científica de la enfermedad de coronavirus publicada en enero por el ministerio

y eso es lo que sabemos pero también sabemos que a partir de ahí se abren incógnitas porque estos síntomas fluctúan en el tiempo y en muchas ocasiones también desaparecen aproximadamente una de cada cinco personas tiene algún síntoma tras cinco semanas de infección y aproximadamente una de cada diez personas mantiene los síntomas semanas de infección y también sabemos que se abren incógnitas porque recientes publicaciones

persistente y en este sentido la sociedad española de medicina general y long covid acts está realizando una encuesta para valorar

como les decía son muchas las dudas creo que mientras las vamos resolviendo es de justicia mandar un mensaje claro a todas las personas afectadas y asegurarles que desde nuestro ámbito competencial allí estaremos incrementando el soporte impulsando seguimiento por especialistas en la materia realizando las pruebas complementarias que necesiten dándoles también soporte emocional e impulsando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

pacientes del covid persistente o representantes de la asociación también bienvenidos a esta cámara aunque la verdad es que no hay manera de poder en esta materia hacer un debate que pueda ir más allá del conocimiento y de los estudios técnicos la ciencia

hemos tenido que acudir a expertos o a la detenida lectura de una realidad que está ahí pero a la que muy poco más podemos añadir desde nuestro punto de vista nuestro conocimiento o nuestra visión política

además se trata de una posible patología muy reciente de la que no se tiene suficiente información como para poder evidenciar nada más que especulaciones

es cierto que hemos asistido en este parlamento a escuchar a varios afectados

más cercana a la realidad del momento pues ahora es una secuela larga de covid y para nada se puede hablar de permanente todavía pues los primeros contagiados fueron hace poco más de un año también es cierto que escuchando a los afectados por esta neopatología nos trasladaron un cansancio y hasta una cierta desesperación

lo que siempre según ellos les limita en determinados aspectos de su rutinaria vida o de su vida rutinaria no pudiendo recuperar la normalidad de su anterior vida a la patología

por centrar el tiro y para dar algunas pinceladas y que así de paso el auditorio conozca y aproveche su estancia en este pleno para aprender algo

tiene un espectro clínico muy amplio sabiéndose que aproximadamente el ochenta por ciento de los infectados experimentan una enfermedad leve el catorce por ciento enfermedades graves con disnea hipoxia y neumonía bilateral

la presentación clínica más frecuente del covid es una infección respiratoria leve y con menor frecuencia una neumonía con fiebre tox y disnea

el veinte treinta por ciento de los hospitalizados con neumonía han requerido cuidados intensivos

agudo con linfopenia aguda alteración de pruebas hepáticas y coagulación incremento de proteínas reactantes en fase aguda

exagerada de citoquinas los que

miedo a la enfermedad que no sigan escuchando hasta aquí la realidad contrastada de lo hasta ahora conocido sobre la interacción entre la fisiología humana muy conocida

todavía francamente desconocido y a partir de aquí las primeras aportaciones de la ciencia todavía no suficientemente contrastadas esta respuesta

es la que puede contribuir a empeorar la resolución de la neumonía y parece que además favorece el desarrollo de manifestaciones que puedan tener una duración patológica y sintomatológica

que no por falta de voluntad sino por falta de tiempo conocido de esta posible enfermedad y de falta de suficientes datos para poder concluir de una manera científica

y alteraciones funcionales semanas o meses después de la resolución de la infección vírica pero todo esto no es suficiente ya previamente a esta pandemia se había descrito en la bibliografía un síndrome postsars cov sars cov en término genérico no el sars cov bi

depresión y alteraciones del sueño por otro lado la casuística que cuentan quienes dicen que no terminan de estar curados son muy diversas

dolor muscular ansiedad y así hasta doscientos síntomas diferentes

un virus cada vez más conocido pero todavía con comportamientos desconocidos que ocasiona una enfermedad con una cantidad enorme de variantes en su ataque al ser humano no todavía suficientemente descritos y estudiados con unas permanentes actualizaciones de los protocolos de actuación en los sistemas de salud

sometidas a debate científico y que provoca una cantidad enorme de síntomas tiempo después de haber pasado la enfermedad incluso en personas que no está comprobado que le hayan pasado provoca lógicamente un gran desconcierto

virus que apareció en china solo la ciencia la técnica la observación detenida el análisis sosegado y el tiempo suficiente para poder sistematizar

las diferentes realidades de los comportamientos del virus y de sus diferentes reacciones

averiguando los posibles remedios para atemperar sus virulentos ataques y los métodos para diagnosticar lo que ha venido en llamarse

síntomas provenientes de una larga recuperación de la patología inicial de aquellos que supongan una nueva patología diferenciada de la infección inicial por eso

además de trasladar sinceramente nuestra empatía a quienes sufren todos estos síntomas porque lo sufren

entendemos que continuar incrementando el soporte ya en marcha para el seguimiento a todas y todos los pacientes que presenten secuelas y persistencia en síntomas de covid diecinueve es la manera más segura

es continuar acumulando datos para mejorar el conocimiento de lo que está ocurriendo en la postinfección al tiempo entendemos y así lo proponemos en nuestra enmienda

un seguimiento específico con profesionales de diferentes ámbitos la realización de pruebas complementarias para su correcto diagnóstico así como un seguimiento y soporte emocional al tiempo de promover proyectos de investigación sobre la persistencia de síntomas de pacientes de covid seguramente no es la solución definitiva

con los conocimientos y recursos de que ahora disponemos para abordar las nuevas consecuencias de una patología casi desconocida provocado por un virus todavía muy poco conocido al tiempo me consta que el departamento de salud se mantiene

y recientemente les ha comunicado que han solicitado a los equipos de investigadores de osakidetza de todo el sistema de salud que expresamente presenten proyectos vinculados a la covid persistente

como para la convocatoria de proyectos vinculados con covid diecinueve financiables con los fondos recaudados precisamente

asimismo han recogido una propuesta de la propia asociación para que el biobanco vasco colabore en la recogida de muestras necesarias para el establecimiento de nuevas líneas de investigación

sabemos que un paso importante a dar sería la del reconocimiento del long covid como una patología pero los datos obtenidos

formalmente le corresponde a la oms de hecho la oms en el cie en la clasificación internacional de enfermedades en su actualización

dentro de un llamamiento para indagar en su conocimiento e investigación reconociéndolo como algo nuevo

mientras tanto se trata de continuar investigando de incrementar las bases de datos de profundizar en la atención de las y los pacientes con sintomatología diversa

están dedicando tiempo y esfuerzo a la materia lo sabemos y sabemos con seguridad que lo continuarán haciendo eskerrik asko

entre los pacientes con secuelas atribuibles al coronavirus parece que se distinguen

los que sufren daño orgánico en su mayoría de tipo pulmonar neurológico cardiovascular incluso ictus y aquellos que sufren síntomas como cefaleas cansancio palpitaciones falta de concentración etcétera

covid persistente yo no me voy a reiterar en los argumentos explicados por diferentes grupos a la hora de describir la patología

pero de la que efectivamente queda aún mucho por saber la sintomatología que incluye es muy variada como ya se ha dicho cambiante y aún no ha pasado un período lo suficientemente largo para saber si desaparecerá con el tiempo

hace que en la literatura científica no haya aún datos suficientes sobre el porcentaje de pacientes por ejemplo que sufre este tipo de secuelas pero es obvio que existe

y que hay que abordarla desde la sanidad pública la iniciativa de euskal herria bildu creemos que busca esto y responde en nuestra opinión a la necesidad y planteamientos expresados por las y los afectados

en asociaciones a los que yo también aprovecho para saludar desde aquí en nombre de nuestra coalición y a los que ya pudimos escuchar hace meses en la comisión de salud en este

matices sobre la iniciativa planteada pero desde luego nuestro grupo comparte tanto la explicación que aborda la señora ubera en su justificación como la parte dispositiva de la

porque vamos a apoyar la iniciativa con nuestro voto afirmativo con nuestro voto a favor sí que le vamos a pedir a la señora ubera

a ningún tipo de acuerdo hacía referencia a la sociedad española de

del ministerio del informe del ministerio la sociedad española de medicina general y de familia presentó ya en noviembre del año pasado una encuesta una encuesta

en valor a dos mil personas que sufrían síntomas compatibles con la covid persistente

sufrir cansancio y abstenía dolores de cabeza musculares falta de aire falta de concentración

de esa encuesta es que en una escala en la que cero es ninguna incapacidad y diez máxima incapacidad la puntuación

sufrir es del cuatro coma ochenta y dos por ciento por lo tanto

está afectando y les hemos escuchado a los afectados está afectando a la vida ordinaria

muchos casos con dificultades para una cuestión que es fundamental como

para seguir adelante es verdad que quedan muchas respuestas por conocer a la hora de afrontar esta cuestión pero es obvio que osakidetza tiene que hacer el mayor esfuerzo y el departamento de salud

el seguimiento el tratamiento la investigación la formación de la covid persistente más allá incluso del debate sobre el reconocimiento de la misma como enfermedad

su importancia y creemos que es necesario ya que hay dos elementos suficientes y las comparaciones suficiente la señora ubera

como para que nosotros también pudiéramos hacerla por nuestra parte por lo tanto como decía vamos a apoyar la iniciativa con nuestro voto afirmativo

ezer gutxitarako balio dute bai eta asko hitz egin da del soporte emocional pues está muy bien pero

gracias señora presidenta simplemente en primer lugar para apuntar

desde un punto de vista maximalista creo que no lo hemos hecho ninguno de los grupos y se lo aclaro para que no le quepa ninguna duda

por aclarar y en ese sentido iba esa definición yo creo que queda un poco

todo de que no se hace una declaración

cuando realmente esta sería una declaración que no tiene nada más de simbólica porque ni este gobierno ni ningún otro ese que determina si una sintomatología específica

no somos los parlamentos los que determinamos lo que es una enfermedad o no y yo creo que eso es simple

de que no hay ni siquiera no si es que no nos corresponde a nosotros de momento lo que hay es una declaración oficial a través de ese documento oficial de información científica de enero publicada por el ministerio de sanidad como un síndrome

por tanto realmente lo que digamos en este parlamento sobre la determinación científica de una enfermedad de una sintomatología no aporta

queda fuera de este ámbito yo creo que se continúa avanzando

diferentes noticias que hemos podido ver en los últimos tiempos en diferentes grupos de trabajo

atención y seguimiento que además tienen como objetivo el hecho de incorporar diferentes protocolos

y un primer paso fue ese documento oficial de información científica de enero al que he hecho referencia que recogió directamente aquella información que es trasladada desde la sociedad española de médicos generalistas de familia y desde la propia asociación

yo no creo que haya mayor reconocimiento siempre lo he dicho que poner medidas encima de la mesa y vuelvo a decirlo en nuestra enmienda lo que estamos haciendo es poner enmiendas por lo tanto reconocer poner medidas es decir reconocer un hecho

en nuestro ámbito competencial tenemos cosas que hacer y voy a repetirlo para que no quede ninguna duda porque no quiero que se dé a entender que este gobierno como se ha dicho

que se impulse el seguimiento en consultas de los distintos especialistas que tienen relación con esas secuelas que se hagan pruebas complementarias

aquel que puedan precisar e impulsar proyectos de investigación precisamente desde la atención primaria estamos dando medidas

y lo vuelvo a decir y con esto acabo según vayamos conociendo más cosas tanto de la covid persistente como de la covid en general se irán adoptando
todas las medidas que sean oportunas y en coordinación siempre con el ámbito de la ciencia nada más y gracias eskerrik asko rico jauna

voy a ser muy rápido porque tampoco el debate da para más quiero decir que

no lo reconocen la enfermedad dice que todavía no puede concretar otra cosa es que es verdad no parece que lo solucionamos reconociendo de no sé qué manera la enfermedad

reconocer una enfermedad es mucho más complejo ni la oms lo ha reconocido usted ha dicho el parlamento navarro sabe lo que ha hecho el parlamento navarro decir que existe y el departamento de salud ha creado un registro es todo lo que han hecho

seguramente ya tendrán un registro o estarán preparado un registro pero no se hace aquí eso lo hace el departamento de salud

una relación ya más o menos rutinaria con la asociación de afectados ellos trabajarán y a partir de ahí eso es lo que eso es lo que está ocurriendo todo lo demás en toda la documentación técnico científica que yo he podido leer y con mi escasez de conocimientos he podido interpretar

que el hecho de que haya un grupo de personas que acumulan una sintomatología más o menos común pero enormemente amplia y dispersa

las últimas informaciones técnicas es que bastantes de los afectados por eso en cuanto se han vacunado se les han acabado no

ahí no tengo una evidencia científica tengo solo una evidencia periodística

las volcamos las evidencias periodísticas como evidencias científicas y nosotros nos parece bien si quieren votar por puntos vamos a votar a todos que no pero no porque no estemos en unos de acuerdo y en otros no simplemente

vamos a perder la posibilidad de aprobar la nuestra que creemos que es la eficaz la eficiente

esa es simplemente la cuestión y por último señora garrido ha citado así de paso no sé qué ocurre que no se puede llegar a un acuerdo

ayer ayer aprobamos una proposición no de ley de materia de salud por unanimidad en este parlamento por unanimidad ayer se aprobó luego existe porque en el fondo y ahora voy a aprovechar un segundito

apelando a las palabras que ha dicho esta mañana fuera del contexto del debate el señor gordillo

por qué no se aplican ustedes el cuento por qué no

ustedes con bildu porque hacen acuerdos a escondidas y no han firmado todavía ninguna transacción la de hoy podían haberla firmado perfectamente

mírenselo qué es eso de hacer el vacío a otros grupos o no no

en la interpelación que realicé hace unas semanas a la señora tapia parece que no se quiso entender y se quiso hacer ver como que yo desconocía los problemas del

resueltos inmediatamente pues bien me veo

y otros lugares debemos evitar situaciones que ya hemos vivido antes y dejar de echarnos las manos a la cabeza por no haber actuado a tiempo y todos los aquí presentes sabemos a qué me refiero

que las desarrollan no han sido suficientes hace falta mejorar el control de este tipo de vertederos por lo tanto

el gobierno no tiene la obligación es culpa de la empresa ellos nos tienen que comunicar eso está muy bien

pero esto no soluciona los problemas que se crean en caso de que las empresas no cumplan con sus obligaciones informen

así que señores algo tenemos que cambiar hoy venimos otra vez a mostrar nuestra preocupación por lo que ha venido sucediendo en zalla en el vertedero de las lagunas

podía representar respecto a la política de gestión de residuos del gobierno vasco ya lo hice saber en mi interpelación nosotros vemos muy positivo el plan de prevención y gestión de residuos dos mil treinta especialmente

los residuos que llegan a vertedero o por esas líneas de actuación en particular la posibilidad de activar un canon de vertido o incineración de residuos que tendría por finalidad evitar que resulte más barato verter

no es algo novedoso la legislación estatal lo preveía desde hace ya varios lustros la novedad es que por fin nos planteemos

por ejemplo todas nuestras comunidades autónomas vecinas esos son los planes los anuncios del gobierno otra cosa es el día a día la realidad

y vuelvo a repetir lo dije en su día estamos ante un vertedero mayor que el de zaldibar hablamos de incumplimientos y de desviaciones graves del cumplimiento bajo de la autorización ambiental integrada durante meses y más meses un incumplimiento que persistía cuando la señora consejera hacia el anuncio del nuevo plan de prevención y gestión de residuos

supuso el cierre o reducción de la actividad del vertedero hasta solventar esas deficiencias si se produjo fue inapreciable de hecho los datos indican lo contrario un fuerte incremento de flujos de residuos hacia las lagunas

extraordinarias y limitando en dos mil veinte y dos mil veintiuno

económicos y por eso con independencia de lo que suponga el nuevo plan que ya debatiremos el gobierno vasco tiene la obligación de corregir y sancionar situaciones

que en este caso no existió los riesgos de todo tipo que un grado bajo de cumplimiento de la autorización ambiental integrada representa no pueden permanecer en el tiempo y sobre el territorio durante meses y meses quienes incurren en tales prácticas empresas o personas físicas deben sus responsabilidades y no parece lógico esperar a que suceda algo grave para exigirlas hablamos de una materia en la que precisamente la prevención es fundamental

las preguntas que realizamos en la interpelación pasada y que no fueron respondidas qué otros vertederos vascos presentan un grado bajo de cumplimiento de la autorización ambiental integrada

o van a seguir actuando como hasta ahora detectado deficiencias acumuladas durante no se sabe cuántos meses o años

tenemos la impresión de que la actuación del departamento ha sido demasiado laxa y que hace falta incrementar las inspecciones para detectar antes los incumplimientos no solo cuando se amontonan

del modo que hemos descrito como también se demoraron en otros vertederos que ya conocemos

es que en unos momentos en los que se incurren en este tipo de desviaciones

de actividad todo ello sin esperar a la aprobación del nuevo plan porque quienes habitan cerca de los grandes vertederos desde hace

viven con temores que antes no tuvieron de la actuación de su departamento del departamento de medio ambiente depende que esos

y para ello necesitamos informes de inspección que reflejen una realidad distinta y también formas distintas de actuar de la administración necesitamos

ambiental integrada por ello hemos querido plantear este debate creemos que es útil

de todos será bueno hacerlo cuanto antes y resulta imprescindible para la credibilidad de cualquier plan de residuos que el gobierno quiera impulsar y nosotros

primero queríamos claridad y certidumbre respecto a la actuación en las lagunas información en sede parlamentaria garantías de que las desviaciones habían sido corregidas por eso planteábamos en el primer punto que el gobierno vasco remitiera a la cámara antes del uno de mayo

así como un informe detallado de todas las desviaciones respecto a la autorización ambiental integrada

en segundo lugar no podemos esperar a reformar las leyes u otras normas para reforzar una inspección insuficientemente dotada para el número de instalaciones y volumen de trabajo que tienen a su cargo por eso planteábamos un plazo

adelantándose a las previsiones del plan de inspección y control ambiental diecinueve barra veintiséis

y por último creemos que un tema de esta envergadura y que viene generando tanta alarma social

y una mayor transparencia por parte del gobierno y por ello pedimos también el apoyo

ante la comisión correspondiente de la cámara a fin de informar sobre las inspecciones realizadas en los diferentes vertederos

les voy a decir que tenemos voluntad constructiva de mirar al futuro y contribuir a mejorar

contar con medios para anticiparnos a los hechos consumados o situaciones límite gracias eskerrik asko larrea andrea

voy a intentar ser breve porque bueno es el último punto y ya llevamos aquí una mañana y yo creo que hasta un poco intensa

de acabar siendo conocido como el contextos me gustaría también en este caso igual que he hecho en el punto número dos poner en contexto esta situación

es necesario levantar la cabeza buscar una perspectiva más general

que es fundamental también a veces hacer ese levantar la cabeza y coger más visión porque escuchando muchas veces aquí las diferentes intervenciones sobre residuos da la sensación de que los residuos son una especie de efluvio divino que nadie sabe ni de dónde viene ni hacia dónde van y es que no vale coger

no vale traer hoy aquí un debate sobre el vertedero de las lagunas de zalla pero pasar de perfil ante las verdaderas causas estructurales que subyacen en el tema de residuos no solo en euskadi

en este debate también tenemos que ser coherentes y tener altura de miras a todos nos gusta llenarnos la boca con la profunda raigambre industrial de nuestro pueblo

de su aportación al crecimiento económico y a la estabilidad del empleo es raro el mes en que no traemos a esta cámara alguna iniciativa que redunde

a la población trabajadora que depende de ella muchos incluso han sucumbido ante la tentación de ir a sacarse una foto ante tal empresa o contra el comité

un modelo industrial que no puede pretender seguir escondiendo la basura debajo de la alfombra en aras a la producción y sus rendimientos

sobre el modelo de economía circular que necesitamos construir en euskadi

que se traduce en una elevada producción de residuos concretamente de los seis coma tres millónes de toneladas de residuos generados cada año sesenta por ciento

el veintiuno por ciento son residuos de construcción y demolición y el diecinueve por ciento restante son residuos urbanos

y no se podrá avanzar en este modelo si las empresas no integran de forma clara y transparente la gestión de desechos como lo que es un coste de producción y en esta reflexión en esta tarea de transformación de modelo es en la que se encuentra inmerso el gobierno vasco porque corresponde a las instituciones utilizar

para que el vertido deje de contemplarse como una primera opción tenemos que conseguir que sea la última salida una vez agotadas las posibilidades de reincorporarlos en el sistema productivo mediante su reciclaje o valorización porque el gobierno vasco

la legislatura pasada se aprobó la estrategia de economía circular euskadi dos mil treinta cuyo objetivo es impulsar la transición hacia una economía más eficiente en el uso de los recursos

también en la pasada legislatura se finalizó la elaboración del borrador del plan de prevención de gestión de residuos del país vasco dos mil treinta que ha dado paso a su tramitación a comienzos de este año un plan que redobla las exigencias de estrategias actuales marcando un nuevo y más ambicioso impulso en la búsqueda de soluciones

es decir el camino por el que tendremos que transitar en los próximos años nos llevará hacia una economía circular concebida desde el diseño de producto hasta la eliminación

para la minimización de la generación de los recursos este es el marco conceptual en el que nos debemos mover cuando queramos hablar de la gestión de los residuos

o de cualquier otro vertedero del que queramos hablar en esta cámara y en el último

la verdad es que tenemos el tema bastante agotado

lo que ya ha dicho el pasado pleno de control el cinco de marzo la señora consejera la señora tapia

que he considerado pueden ser o han quedado suficientemente zanjadas efectivamente en visita de la inspección de junio de dos mil veinte se detectaron once desviaciones poco relevantes y seis desviaciones moderadas esa es la clasificación que le otorgaron los inspectores durante la visita es una clasificación y ni se la puso la señora consejera ni la señora viceconsejera

no nos queremos dar cuenta que en nuestro legítimo derecho al juego político con declaraciones voluntaria y premeditadamente superlativas lo único que hacemos es poner en cuestión el trabajo de los técnicos y las técnicas del gobierno vasco insisto

y el treinta y seis por ciento restantes moderadas la gran mayoría de carácter administrativo

de once de las desviaciones es decir de dos de cada tres detectadas la administración cumpliendo su función de inspección y vigilancia siguió requiriendo a la empresa la subsanación de las desviaciones restantes

en cuanto a los incendios que también fue referido durante la interpelación

con todo tipo de detalles en dicha ocasión y una vez más y por abreviar también este último punto de la sesión me remito directamente al diario de sesiones aunque sí quisiera tocar un par de cuestiones al respecto tras los diferentes incendios ocurridos durante los años dos mil diecinueve y dos mil veinte

una serie de estudios y mediciones a fin de determinar las dimensiones del problema con fecha catorce de octubre se aprueba por parte del gobierno vasco el plan de acción presentado por la empresa a consecuencia de ello

así como la excavación del área afectada y la reparación de geomembranas y en ello siguen a fecha de hoy

sumamente interesada que lo único que persigue es esquivar el fondo

sin embargo me alegra el que hayamos podido llegar a una transaccional entre el partido popular ciudadanos partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi euskadiko ezkerra una transaccional que de alguna forma lo que intenta es valorar ese contexto intenta

a reforzar las labores de inspección del gobierno vasco a reafirmar el compromiso de transparencia y claridad abriendo la información a la ciudadanía apoyo a las políticas y a los objetivos del plan de prevención de gestión de residuos o fomentar el reciclaje y la valorización e impulsar el canon de vertidos

incineración que son unos puntos de alguna forma que quedan recogidos en esta transaccional que lo que hace

hacia lo general hacia las necesidades más generales en esta cuestión de la gestión de residuos y deja un poco aparte

del vertedero de las lagunas de zalla nada más muchas gracias eskerrik asko alonso jauna euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

y que es un vertedero que dispone de su autorización ambiental y que según dicha autorización aún no se ha acolmatado y que por lo tanto

y preocupaciones entre comillas pues es normal que se siga llenando todo eso y más cosas le respondió la señora consejera señora larrea pero en su moción y hoy mismo lo ha repetido

todas sus preguntas fueron insuficientes y yo quiero creer que la opinión sobre la insuficiencia pueda ser tan sincera como el nivel de preocupación que algunos

hemos llegado a una enmienda de transacción creo que es una buena enmienda de transacción es una enmienda de transacción con muchos puntos y mucho contenido y que por lo tanto bueno invitaría a todos los grupos presentes en la cámara y a pesar

a votar si no es en su globalidad cuando menos por puntos eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko arratsalde on el vertedero de zaldibar del vertedero

son nombres de instalaciones de gestión de residuos que han ocupado

cámara demasiados y generalmente no muy positivos y por nuestra parte

pretendido por ejemplo de una iniciativa particular que se hablaba de zalla también intentar ampliar el foco como se ha hecho también en la enmienda que se ha firmado hoy hablar evidentemente una pnl no va a resolver la política de residuos puede ayudar pero sí que ampliar el foco en la gestión

que esperemos que pase también por esta cámara la generación de residuos en euskadi alcanzó en el año dos mil dieciocho seis coma uno millónes de toneladas

seis por ciento se incinera es decir un cuarenta y tres por ciento de los residuos ni recicla ni se

aumenta todavía más de esas cifras el vertedero de zalla acoge muchos de esos residuos tras el cierre además del vertedero de zaldibar pero también del cierre de mutiloa y larrabetzu el vertedero de zalla ha empezado a recibir muchos más residuos que antes

en apenas dos años en euskadi y estoy de acuerdo también con alguna reflexión que se ha hecho es un país que se consume mucho y que se generan muchos residuos tanto urbanos como industriales y no es que este año tengamos un problema con la gestión de residuos en euskadi sino que es un proceso que llevamos tiempo por la gestión que se ha llevado durante las últimas décadas de esta política por parte de los sucesivos gobiernos pensamos y así lo hemos dicho

plazo de los distintos gobiernos ha provocado que en euskadi haya una proliferación de los vertederos y de las incineradoras los verdaderos lowcost iba a decir la incineradoras lowcost estas no tanto con costes

de los residuos que casi ninguna empresa invierte en dar una segunda vida a esos residuos verter y quemar en euskadi suele salir bastante barato tras un tiempo de

controvertida de la política de residuos la sociedad no solo los grupos de la oposición yo creo que la sociedad en su conjunto está exigiendo más control mayores requisitos a estas empresas que han visto los residuos de origen industrial principalmente una mina de oro donde obtener grandes beneficios en muy poco

criticando también que es la política de hacer negocio de absolutamente todo probablemente desde el gobierno se bueno lo que hemos leído y lo que hemos escuchado es que

todo a la perfección que se han enviado unos requerimientos de subsanación y que ya fueron subsanados y bueno pues como hemos oído hablar se habla del plan de residuos para dar una respuesta a todo nosotros y nosotras en nuestra enmienda hemos querido ir más allá hemos hablado también ya

y no sé por ejemplo aprovechando este debate y en la ampliación del foco hay dos proyectos que ahora mismo están encima de la mesa la y la gestión también la valorización de los residuos urbanos de araba

se vayan a ejecutar al mismo tiempo hay un debate en bilbao sobre una nueva solicitud de un nuevo vertedero de residuos no peligrosos

recuperar para la ciudadanía con la normativa europea que existe que insiste en que prioricemos el reciclaje la reutilización y la recuperación de los residuos se va a autorizar este

es esta la economía circular eso es lo que queremos saber también en el día de hoy según el plan de residuos dos mil treinta se tiene un objetivo intermedio en el año dos mil veinticinco

es coherente esta planificación con la posible no autorización en bilbao en nuestra opinión y ahí

de residuos y no enterrarlos debajo de la alfombra o quemarlos evidentemente por todo ello en nuestra enmienda instamos al gobierno a no autorizar la construcción de más vertederos en euskadi a hacer una planificación

podemos discutir sobre ese plan y poner en marcha estas instalaciones que estamos hablando y que tan necesarias son de

lo aprovecho ya si se nos permite votar por puntos ese punto por ejemplo junto a otros votaremos a favor llevamos años pidiendo un canon de estas características parece que puede estar este año como mucho el año que viene bueno les animo a que cuanto

más ambiciosos en el cumplimiento de los objetivos y pensamos

como el momento y el planeta exige y el señor alonso ha abierto un debate que es muy interesante y nosotros llevamos mucho tiempo

esto no choca con la competitividad de las empresas a largo plazo la única forma posible

sean competitivas es que los costes de producción como decía el señor alonso en los planes de la economía circular el proceso del ciclo completo del proyecto esté metido en los costes de producción y en lo que generan fuera empresa y evidentemente tienen que ir en la línea de una transición justa para las empresas para los trabajadores pero evidentemente también para los objetivos del país y los objetivos de lucha contra el cambio climático de hecho desde elkarrekin podemos izquierda unida en la sesenta y seis propuestas que hicimos en el debate monográfico de los fondos next generation hicimos varias propuestas en ese sentido

los recintos de recuperación de residuos que hablaba al principio esta iniciativa que trata sobre el vertedero de zalla

un vertedero donde bueno pues ya se ha relatado que hubo determinadas incidencias incendios injustificados poco justificados

tipo de incumplimientos la señora tapia nos respondió que de los dieciséis incumplimientos se envió requerimiento a la empresa el treinta y uno de julio del año dos mil veinte para subsanar esas dieciséis desviaciones y se subsanaron once para el quince de septiembre y las últimas cinco para el nueve de diciembre cinco meses tardaron en

se nos contestó que se resolvieron en treinta días los dieciséis

hay algo que falla treinta días o cinco meses dos respuestas distintas del mismo departamento del mismo gobierno por eso por eso también en nuestra enmienda pensamos que la inspección no solo aumentar la inspección como se hace

aprovechar las nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición para hacer un control continuo también

y de los movimientos y del tipo de residuos y qué empresas están usando esos vertederos por eso hemos propuesto esa mejora también en lo que es

pensamos que hay que ir más allá de la política de requerimientos sin sanciones pensamos y así nos lo dicen también trabajadores y trabajadoras de distintas administraciones públicas

solo en avisos por tanto

ningún acuerdo con el grupo proponente pero bueno hemos estado hablando y estamos de acuerdo con algunas de las partes

que se ha firmado iba en el sentido constructivo de

permitir porque tenemos la tecnología para ello y porque sinceramente si queremos hablar de futuro la única manera que tenemos es que la gestión de los residuos primero empiece

la gestión se haga como el momento actual exige para el vertedero de zalla pero también pensamos

tienen que ser controladas y monitorizadas utilizando como decía la tecnología más avanzada que tenemos a nuestra disposición y además lo pensamos y así también lo hicimos

es un nicho de actividad económica que es muy importante también para el futuro de euskadi por tanto estas herramientas de inspección para tener la información en tiempo real y no esperar a tener que hacer una solicitud de información o que alguien en algún momento lo suba

en tiempo real está a disposición de con una inversión que probablemente sea considerable pero a largo plazo será una inversión

por tanto como decía votaremos por puntos si así nos dejan de acuerdo evidentemente por supuesto con recibir la información faltaría más cómo vamos a estar en contra de eso pero por eso pedimos más transparencia y una gestión

sobre el plan no podemos avalar ese plan sin que haya pasado por la cámara por tanto daremos también nuestra opinión concreta

más control y sanciones para que no sea rentable tirar residuos sin más

el señor contextos me lo ha puesto a huevo no claro nosotros tenemos la cabeza en el balde usted

cuando pone el contexto se olvida de decir la mitad de las cosas coge usted lo que le da la gana y entonces claro

entrar un poco también en el contexto tal vez desde ángulos que usted no ha querido

es que entre todos consigamos terminar con la situación actual es decir la situación actual está lejos lejísimos de ser una situación buena o normalizada

de lo que había que hacer que no tengamos que llevar nada fuera reconocemos que estamos llevando fuera hay que ir reduciendo estamos generando mucho hacen falta desarrollos legislativos

porque está resultando muy barato llevar a vertedero hay que incrementar los recursos de inspección y sanción porque no llegamos a inspeccionar y sancionar debidamente

que nos permita garantizar el buen hacer de la gestión de los residuos klaro hori da ezta aipatu nahi nuen beste kontua la garantía del buen hacer en la gestión de residuos

muchos años de política muy condescendiente con la industria de mucho requerimiento

cuando necesitamos con urgencia una política conservadora del medio ambiente y de la salud y la cuestión para mí no es tanto que también si vamos a tomar unas medidas u otras hacer unos planes u otros unas leyes

que todo habrá que hacer si no si vamos a exigir desde aquí al gobierno que cumpla que cumpla con su obligación

sus derivadas y en las sancionadoras también porque la administración ambiental no puede ser

un instrumento bajo impulso político que en última instancia lo que busca es facilitar la competitividad empresarial externalizando costes a base de relajar el rigor ambiental y los funcionarios públicos

las labores de inspección de vigilancia de sanción no pueden estar al albur

o de los mandatarios de turno porque esa es precisamente la esencia del funcionariado

pero en estos últimos años se ha creado un entorno que ha sido bastante perverso una sensación de impunidad que es lo que estaba que está detrás de zalla detrás de zaldívar y detrás

negativa reiterada en el medio ambiente y el de zalla lo que viene a ser es un ejemplo más un ejemplo más como un ejemplo fue zaldívar o tantos otros que están existiendo

que están detrás de los grandes problemas de los vertederos ez hori bakarrik ez hori bakarrik gero dago

puntu interesgarri bat eta da que se refuercen los recursos humanos

vicesailburu elena moreno la legislatura pasada lo dejó meridianamente claro una y otra vez

para sancionar las empresas que están incumpliendo las leyes medioambientales

pues apaga y vámonos amaitu mesedez bai barkatu y al final

y han aprobado un montón de cosas que ya vienen dadas

porque creo que en el punto dos pone claramente

tranquilamente el hecho de reforzar la manera de inspeccionar los vertederos

partidos firmantes de esta transacción quiero hablar de la preocupación como ha dicho la señora arrizabalaga

venir a esta sede parlamentaria y aportar inquietudes que vayan a mejorar las normas y vayan a mejorar las leyes y vayan a mejorar

y mejorar y siempre lo he repetido en mi primera intervención desde un ánimo una voluntad constructiva de mirar al futuro

y para evitar desastres futuros y contextualizando

que el contexto era el hecho de

y que dentro de la necesidad de la existencia de vertederos es importante la labor de control y la labor de reciclaje de todos esos vertidos por lo tanto creo que sí ha sido fructuosa la negociación con respecto a esta pnl que ya somos firmantes de la transacción y

reducir a menos del quince por ciento los que van a vertedero activar inversiones prioritarias que minimicen el vertido

todos estos objetivos activar un canon de vertido e incineración

crear una instalación pública privada para la gestión de los residuos a apoyar soluciones definitivas para plásticos fomentar la compra pública y privada verde prevención y fomento de reutilización y reciclaje de alta calidad de envases plan de recogida y gestión de fibrocemento estructural etcétera aztertuko ditugu

mesfidantza gutxiago ezkortasun gutxiago críticas demoledoras a mansalva tenemos todavía más que residuos pero por qué no

barkatu portavoz de podemos dice treinta días o cinco meses bueno

pero la señora consejera dijo nueve de diciembre saque la cuenta y seguro que es verdad porque además detalló todo el itinerario

muchos titulares en el tema este de las basuras y los residuos y tanto que sí es uno de mis temas preferidos ya

que llevamos media vida discutiendo casi todo no voy a decir que todo

casi todo en balde es decir de todos esos titulares muchos muchos hubieran sobrado si no fuera porque detrás tenían una clarísima intencionalidad política reconocible eta gero ba

komentatu nahiko nituzkeenak dejar atrás la política de subsanación y lees eso y dices cómo es posible si la propia ley toda la normativa no solamente la nuestra todos los niveles

si todo el mundo considera que la medida más eficaz en cuanto a la protección del medio ambiente más allá de la tramitación de expedientes sancionadores a medio plazo al plazo que establezca la normativa administrativa más eficaz es la política de subsanación no autorizar más vertederos el proyecto del nuevo plan de prevención y gestión de residuos dos mil treinta del que hablaba es ambicioso y lo he dicho y lo es en muchas cosas lo he dicho y también en su intencionalidad de no habilitar nuevas zonas de vertido

y de una forma un tanto retórica aunque entiendo que es difícil quizás de entender

por escrito sin ningún tipo de contexto pero yo se lo explico

de acabar con la política de requerimientos de subsanación estamos hablando de lo que he dicho en la primera parte

que es que prácticamente no se sanciona a nadie no estamos hablando de que se sancione porque sí sino que

jamás a la política de sanciones que está llevando y ha llevado durante mucho tiempo a

con la gestión de residuos en esos vertederos pues eso es lo que estamos hablando con la finalización de la política de requerimientos de subsanación que tienen que seguir su procedimiento obviamente pero

eternamente la política que se esté llevando a cabo en cuanto a las fechas de la señora tapia

pretendido ilustrar con esas dos respuestas de la señora tapia que había una incoherencia entre los treinta días y los cinco meses que sabemos que son en una parte de treinta días para última subsanación

inspección que tenemos nuevas tecnologías a disposición de lo público en este caso del gobierno vasco para mejorar la inspección que se hace en los vertederos

qué están vertiendo en cada momento y que eso prácticamente en tiempo real podría estar monitorizando por el gobierno eso es lo que estamos reclamando y por eso nos parece que es poco

lo dicho entiendo que por las palabras que he oído nos dejarán votar por puntos

usted tenía una propuesta interesante a mi modo de ver que era la de reforzar en concreto era reforzar los recursos humanos y materiales y hablaba de rpt y hablaba de unos plazos

a lo que usted proponía y es algo además que me da una pista

de prevención y gestión de residuos sí se habla de reforzar

sostienen al gobierno aprobar o apoyar esa enmienda o dejar eso más explícito con lo cual ya me estoy temiendo que tanto apoyo a la inspección

inspección y sobre el impulso sobre la labor que tienen que hacer los funcionarios

me voy a ir a una de las últimas resoluciones o consideraciones del ararteko que lo ha hecho a través de otra cuestión de una petición sobre un tema relacionado con petronor pero me da igual no voy a hablar de petronor

de modus operandi de práctica sistemática que es lo que venía yo a decir como crítica principal vale las referencias cuatrocientos tres veinte veinte cu ce del veinticinco de marzo o sea

y lo que viene a decir el ararteko que dice algo bien interesante después de hacer un poco un análisis de las leyes y cuando habla

de la directiva europea dos mil diez que ustedes han mencionado en su

después de hacer todo el análisis después de explicar cómo las funciones de

por lo tanto jaurlaritza el órgano ambiental lo que dice las actuaciones de inspección son la base del inicio de las otras potestades de disciplina ambiental como son la potestad sancionadora etcétera etcétera

la obligatoriedad del ejercicio de estas potestades para las administraciones públicas es una consecuencia ineludible del principio de legalidad y de la interdicción de la arbitrariedad que deriva del artículo nueve punto tres de la constitución y sigue por este motivo

reglado ya que constituye un deber para los órganos competentes de la administración la persecución de las infracciones administrativas y alude a una

que dice que las competencias también en esta materia son irrenunciables y deben ser ejercidas con sujeción al principio de legalidad por el órgano que las tiene encomendadas y concluye

en una inspección de un hecho infractor recogido en la normativa medioambiental como el caso de incumplir las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada y de aquí me voy de petronor a zaldibar y a zalla

el órgano competente de la administración tiene la obligación

ya que en este ámbito no hay discrecionalidad administrativa no hay discrecionalidad no se puede decidir que no se sanciona y esto está muy claramente tipificado porque el texto refundido

repartir las competencias habla de las infracciones y dice que es una infracción grave incumplir las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada aunque no se haya producido un daño es grave y ustedes me hablan

de leves y moderadas y tal no hay tipificación de leve moderada es una infracción

y además en caso de infracción grave se explica las multas las clausuras temporales o lo que se tenga que hacer y es un procedimiento reglado

este gobierno lo que está haciendo es pasar ese procedimiento reglado ineludible a un procedimiento discrecional que depende del impulso político de los intereses de los partidos que gobiernan este país